muchas gracias señora presidenta señorías miembros del gobierno señor lehendakari miembros del gobierno el pasado doce de noviembre presenté ante
cámara le presenté a la señora consejera de autogobierno una interpelación relativa a la necesidad en nuestra opinión en mi opinión de que

reformas en nuestra legislación destinadas a garantizar la protección de las personas denunciantes la protección de las personas denunciantes es capital en todas las administraciones públicas modernas y en todas las sociedades democráticas avanzadas

mire la cantidad de dinero que se mueve por ejemplo en contratación pública es muy elevada está calculado que en el ámbito nacional a nivel

pero seguramente el porcentaje relativo sería bastante superior es habitual que todos y además viene siendo cada vez más habitual que incluso en el sector privado las propias empresas comiencen a establecer sistemas

con los compliance officer etcétera es decir establecer sistemas internos también para garantizar no solo la legalidad

para proteger precisamente a personas que disponen de una información

destapar posibles situaciones de fraude corrupción etcétera

según un informe que hizo en su momento la comisión europea se calculaba

que la pérdida de beneficios potenciales que sufre la sociedad europea como consecuencia de la falta de protección de las personas denunciantes

millónes de euros podría ser prácticamente incluyendo la depreciación etcétera

de euros anuales para el conjunto de la unión europea no se trata solamente

y se trata sobre todo de que dispongamos o establezcamos unos sistemas para garantizar que los recursos públicos

más eficiente posible y sobre todo a salvo de prácticas corruptas corruptelas etcétera o cualquier otro tipo de circunstancia similar

de corrupción de fraude etcétera y por esto ha habido momentos determinados

ciertas administraciones han tomado la iniciativa directamente de crear precisamente sistemas para proteger a las personas denunciantes

alguna en el caso de cataluña hay administraciones también autonómicas que lo han hecho por ejemplo

o se han aprobado normas en este sentido en aragón también en castilla y león

ciertamente tenemos ya finalmente una directiva una directiva que se aprobó en el año dos mil diecinueve y que corresponde al gobierno como saben ustedes trasponer

antes de que acabe este año natural concretamente antes de mitad

es necesario trasponer esta directiva en el derecho nacional en este sentido yo creo que es importante que todas las administraciones actúen de manera también coordinada y que sobre todo establezcan procedimientos ciertos de coordinación

junto también a instituciones como la fiscalía los juzgados etcétera

es tan corrupto como las normas la situación la sociedad le permite ser y es cierto que en países como el nuestro en sociedades como la nuestra lo que ha sucedido muchas veces es que

destapar casos que al final nos afectaban a todos porque cuando se produce un caso de fraude de corrupción el damnificado somos todos los damnificados somos todos y aquí lo que ha sucedido muchas veces y hablo en general en españa aunque también podríamos poner muchos ejemplos en nuestra comunidad

apartada afectada en sus relaciones personales laborales etcétera y eso es lo que este tipo de legislación y este tipo de actuaciones

tienen que evitar y por eso creo que es importante dar un paso adelante en esta dirección como en parte a continuación lo explicaré

mire en el caso de la protección de las personas denunciantes lógicamente la directiva lo que establece son la necesidad o establece medidas que se establezcan medidas en los distintos estados miembros de la unión que afectarían a distintos sectores del ordenamiento

habría medidas que afectarían al ámbito penal habría que reformar efectivamente cuestiones en el código penal hay medidas que afectarían a la forma en la que funcionan las administraciones públicas y también hay medidas que afectarían

entre distintas administraciones públicas garantizando también garantizando también una cuestión muy importante que es sobre todo la en este caso

la intimidad y sobre todo el que no se tenga conocimiento de qué persona ha podido ser la persona denunciante en casos determinados y facilitando en caso de que sí que

de posición laboral o que pueda digamos reconstruir también su vida su vida profesional de la manera menos traumática posible porque si no no hay incentivos si no no hay incentivos

la manera que existe o que tienen los ordenamientos señorías como seguramente ya sabrán para fomentar o para incentivar que las personas que tengan cierta información la pongan en conocimiento de las autoridades es diversa

en los que incluso se compensa económicamente a las personas denunciantes más de tipo anglosajón en los sistemas de tipo anglosajón además los sistemas luego de rendición de cuentas implica muchas veces

unas multas unas sanciones muy disuasorias porque son unas sanciones

de la proporcionalidad sino que para entendernos señorías serían sanciones ejemplares

tipo de ordenamiento jurídico todas sanción tiene que guardar una cierta proporcionalidad etcétera

para poner en conocimiento de las autoridades pruebas o informaciones de las que dispongan para que se activen los mecanismos necesarios y acabar con este tipo de situaciones cuáles son

pues hombre incentivos incluso se habló en momentos de discusión de este tipo de normativa de establecer premios económicos y tal pero bueno fue descartado en todo caso lo que sí que se establece o hay que establecer son medidas de protección de estas personas qué tipo de medidas de protección pues miren por ejemplo una persona que trabaje en la administración pública tenga capacidad luego de moverse o tenga capacidad de trasladarse por ejemplo de su lugar ordinario de trabajo un sistema que le permita hacer llegar la información

para su identidad es decir que no se conozca finalmente la identidad de la persona denunciante que haya una reserva en este sentido incluso

hay cuestiones que como afectan también a los derechos de defensa de personas físicas y jurídicas afectadas como decía antes hay que llevar a cabo ciertas reformas que van a afectar a todo nuestro ordenamiento siendo esto así en el caso español una vez que se produzca la una vez que se produzca la trasposición de la directiva que

la comisión europea puede establecer lo que se llama un procedimiento por incumplimiento de trasposición en este caso del derecho de la unión y por tanto

en la medida en que hay un cierto margen de maniobra en algunas cuestiones pues sí que es muy necesario que todas las administraciones y todas las instituciones de españa que se dedican

así lo dijeron por ejemplo en las comparecencias de expertos que hubo en el parlamento andaluz con motivo

el pasado junio hubo una serie de comparecencias y por ejemplo la fiscalía sí que dejó establecido que tenía una opinión positiva de la propuesta de ley o del proyecto de ley andaluz pero lo que sugería o lo que sugirió en su momento en trámite parlamentario es que se incluyeran mecanismos de coordinación entre todas las administraciones es decir que

los ayuntamientos las diputaciones forales luego el gobierno vasco y también competencias del propio estado central de lo que se trata insisto es de evitar que las distintas o la complejidad de nuestra administración pues pueda ocasionar problemas o sobre todo suponga un freno para luchar contra este tipo de situaciones bien esta es la situación es por eso que el día doce el otro día

la interpelación que ya todos ustedes conocen claro ahí lo que se planteó o el debate que tuvimos fue muy interesante y constructivo señora consejera aprovecho para decírselo en el debate que tuvimos claro el argumento que me daba

no era malo bueno vamos a esperar a que se trasponga la directiva nacional la directiva perdón europea a derecho nacional y a partir de ahí actuaremos bien

es un poco un cambio respecto de otras veces que hemos legislado en el país vasco a veces sin esperar del todo a que se lleven a cabo ciertas medidas pero bueno

y esperar efectivamente a que se lleve a cabo esa trasposición

porque una cosa yo creo que tenemos que ir teniendo ya bastante clara y es que

va a pasar seguramente por la aprobación de leyes en todos los parlamentos autonómicos que incluyan el establecimiento la designación la composición o lo que fuera de una

que goce de la máxima independencia y que sea el que acabe finalmente digamos analizando este tipo de situaciones y de denuncias pero bueno ese es un paso posterior por eso yo creo que el mejor sistema

no es que traigamos o que traiga yo aquí un día una iniciativa que pueda parecer más o menos interesante y que se quede en una iniciativa

en la propia administración y que sobre todo entre todos vayamos cambiando poco a poco lo que es también la cultura social en este tipo de cuestiones por eso el procedimiento o lo que nosotros pensamos era plantear la interpelación a continuación someter a esta cámara la necesidad de que el gobierno considerara efectivamente el aprobar una ley

a lo mejor propondría también a consideración de esta cámara una proposición de ley en este sentido pero yo creo que el camino adecuado sobre todo una cuestión tan delicada

es que la iniciativa provenga de un proyecto de ley del gobierno que venga acompañado de todos los informes jurídicos

toda la seguridad la seguridad jurídica y sobre todo

con el resto del ordenamiento lo que tenga que modificar y sobre todo que son conformes también con la propia directiva por eso señorías se trata de avanzar yo creo que hoy quizás un paso modesto pero es un avance en este sentido porque el acuerdo al que hemos llegado con los partidos que sustentan al gobierno es esperar efectivamente a que se produzca que es inminente la transposición de la directiva a nivel nacional a nivel estatal y a continuación que el gobierno analice esa directiva y que informe a la cámara y hombre yo ahí espero

se suscite la necesidad de presentar un proyecto de ley en este sentido porque yo creo que es necesario por eso yo creo señorías insisto y con esto acabo

y hoy creo que podemos dar un paso en esta dirección y por fin establecer un sistema que nos homologue con el resto de administraciones europeas y un sistema

en última instancia los servicios que recibimos los ciudadanos estén convenientemente protegidas muchas gracias eskerrik asko gordillo jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen

agencia de prevención y lucha contra el fraude y la corrupción de la comunidad valenciana

y todas estas oficinas contra las malas prácticas y la corrupción tienen canales de denuncias como los que hoy estamos planteando aquí que cumplen los requisitos de la directiva europea de whistleblowing y ahí es donde la iniciativa original transaccional que ustedes van a aprobar hoy aquí se queda coja se queda muy coja porque quién va a gestionar estos canales quién se va a encargar

prácticas irregulares sin tener que acudir a la justicia ordinaria con lo que esto supone

con el desarrollo de esta ley pero no nos ha hablado ante qué autoridades y para nosotras esa es la clave

un organismo no tener una autoridad que pueda establecer

y regular estos canales en cumplimiento de esta directiva supone renunciar a la detección y prevención de infracciones en una fase temprana no tenemos

en fases tempranas supone también no promover el cumplimiento normativo mediante el establecimiento de canales de denuncia eficaces confidenciales y seguros que protejan eficazmente precisamente a los alertadores de las represalias y no

no establecer mecanismos para que los alertadores no incurran en responsabilidad alguna ya sea civil penal administrativa o laboral en el mayor caso de corrupción que conocemos en este país que está pendiente de una sentencia firme ya sabemos las represalias que la persona denunciante ha sufrido y ha tenido eta beraz

politikoak dira dos elementos destacables el primero de ellos es esa renuncia otra vez que se hace a una actitud proactiva para detectar y perseguir

y la otra renuncia es por qué no hacer uso de nuestras competencias y esperar a lo que haga de españa y pasa un poco aquí como con la ley que presentamos para la limitación de los precios de alquiler es decir tenemos un problema podemos solucionarlo tenemos herramientas para hacerlo pero no pero vamos a esperar a una hipotética ley en este caso a una hipotética transposición de la ley que veremos cuándo llega pero mientras tanto los precios del alquiler están por las nubes y no les ponemos coto y mientras tanto no tenemos canales seguros para poder denunciar este tipo de prácticas irregulares

la verdad es que ustedes empiezan a tener empiezan a tener una acumulación

solamente esta legislatura ahora que se remueve señora garamendi de su escaño esta legislatura ustedes

en la enmienda transaccional se recoge y en su caso y si ya veremos

gracias presidenta bueno yo voy a ser bastante breve fundamentalmente porque

se explica yo creo que por sí solo y además responde a algo que cuando subimos a un atril como este

por sí sola tenemos por un lado una directiva europea de la que ya se

es esta la tenemos todos hemos accedido la hemos visto sabemos que no solamente habla del tema del que hoy nos estamos centrando sino que abarca algunos ámbitos más

estados miembros existe una previsión existía una previsión

anunció que será incluido para pasado este año en los comienzos del próximo año luego explicaré que no

estos retrasos de hecho está siendo la tónica general en toda la unión europea y daremos la razón de por qué y a partir de ese mandato lo lógico es que después

lógico proceda a los desarrollos que tengan que hacerse sean normativos o no normativos que también los puede haber que esa también es una de las razones por las que tendremos que analizar

de la transposición por lo tanto en realidad no estamos discutiendo sobre el fondo esta es una cuestión más de fuero

el tiempo en este tipo de cuestiones me gusta ser bastante más

y eso es muy importante en la necesidad de continuar implementando los mecanismos de lucha contra la corrupción y también en la protección a los denunciantes y creo que ese es un ámbito compartido por todos

posicionamiento inicial que lo ha explicado el señor gordillo que es lo que vimos el otro día en la interpelación

aváncese desde el ámbito autonómico sin esperar a la transposición del ámbito

me va a permitir porque no es lo que estamos acostumbrados a oírle al partido popular al menos aquí en euskadi

aquí pero fundamentalmente me parece raro porque no es lo acertado y creo que usted y yo lo compartimos en un elemento como este que en sus desarrollos

y eso sabemos que puede acabar siendo así se habla de un plazo determinado y es verdad que ese plazo existe y vencería ahora en diciembre de este año pero está habiendo dificultades yo ayer mismo

para hacer el seguimiento de los países que han hecho la transposición efectivamente es una página oficial que cada catorce días se va actualizando y de momento

uno es el que lo ha conseguido y es que estamos teniendo dificultades dificultades desde el momento en el que se procedió

pero hombre también se nos olvida que por medio pasa una cosa que se llama pandemia del covid

de muchos gobiernos han quedado aplazados precisamente para desarrollar hacer desarrollos legislativos volcados en las necesidades específicas que teníamos para hacer frente a esta cuestión pero sobre todo

el mayor debate que está ampliando estos plazos que deberían ser tenidos en cuenta

el alcance de la nueva legislación más allá de los requisitos mínimos que se establecen en la propia directiva porque como saben y yo creo que el señor gordillo en la interpelación lo dijo

que en las directivas se están dando por lo tanto existen esas además de forma generalizada en la unión europea esos retrasos se están dando y

incluso se habla en foros europeos lo pueden comprobar de la posibilidad de que exista una ampliación oficial de este plazo

es decir volvemos a comentarlo en el fondo estamos todos de acuerdo el gobierno de españa lleva tiempo trabajando

trabajo dentro de la comisión general de codificación para presentar una propuesta de ley sobre la protección de los denunciantes de corrupción

de trabajo el dos de diciembre de dos mil veinte se entregó el primer borrador al ministerio y el siete de enero de dos mil veintiuno se abrió el proceso de consulta previa que se cerró

planteado el señor estarrona y que son necesarias además pero para ver que efectivamente están recogidas también dentro de esa y como les he dicho pues el ministerio está trabajando y este martes en el senado la propia

dijo que estaba trabajando en el anteproyecto que permitirá tanto el reparto competencial en la materia dadas las múltiples cuestiones transversales a regular

de las comunidades autónomas respetando su potestad autoorganizativa es decir vemos que ese timing si me lo permiten

es el timing lógico con el que está trabajando el estado por lo tanto la enmienda transaccional a la que hemos llegado

porque responde a esa lógica inicial que les he intentado al menos exponer en esta intervención

que hice en privado con el señor estarrona el primer punto lo debatimos en junio y en ese mes de junio yo fui

y fui más allá de lo que debe ser una explicación de voto le pedí disculpas en privado se las pido hoy aquí

a lo que ya le dije en el mes de junio y el resto de los puntos los tres puntos son cuestiones que están recogidas dentro de la directiva y que como le digo nosotros compartimos y que tendrán que verse incluso en esa encuesta que le he dicho antes que planteó el gobierno

la consulta pública se puede leer en su punto cinco que concretamente se habla y se hace la pregunta debe crearse una autoridad administrativa independiente encargada de recibir dar respuesta y seguir las denuncias que se presenten por canales externos o deben encomendarse las funciones a una autoridad ya existente ese debate está ahí y lo vamos a tener en el congreso de los diputados

que se sientan en esta cámara por lo tanto yo creo que con la enmienda que conseguimos hoy que es en primer lugar esperar a esa transposición qué es lo que la transposición nos dice y el compromiso del gobierno de informar sobre qué es lo que va a hacer una vez que esto se haya convertido en ley avanzamos

en bajar al terreno esa necesaria garantía de los denunciantes para seguir luchando contra la corrupción yo creo que es un buen acuerdo y quiero

en torno al tema que nos ocupa es conveniente esperar y es lo que acordamos en la enmienda transaccional que presentamos

esperar a que una vez hecha la transposición de la directiva europea por parte del gobierno central esperar a que una vez que hayan sido realizados los cambios legislativos que sean precisos el gobierno vasco

a informar a esta cámara en un plazo máximo de seis meses de las cuestiones que tenga que abordar o modificar fruto de esa transposición de la directiva europea decíamos que merece la pena esperar

en opinión del grupo euzko abertzaleak es necesario imprescindible conocer la regulación que haga el estado en relación con la transposición de la directiva aludida que como bien ya se ha dicho es esa directiva

estamos hablando de una directiva que va a suponer importantes cambios en el tratamiento que los estados miembros dispensan a quienes denuncian conductas ilícitas conocidos como alertadores no es desde luego una tarea exenta de complejidad veremos qué cambios se pueden introducir en la normativa estatal que deberá en nuestra opinión

porque estamos ante un tema que fundamentalmente debe tratarse desde el ámbito de la justicia

primero deben de tener un planteamiento claro los legisladores orgánicos penales y del poder judicial y luego podremos situarnos en el ámbito vasco con mejor criterio

ari dela como les decía veremos qué cambios se pueden introducir

y con ese proyecto de ley que la ministra anunció que va

los informes preceptivos del consejo fiscal consejo general del poder judicial consejo de estado sobre una cuestión que evidentemente tiene su complejidad jurídica

esperar a esas novedades legislativas no quiere decir que no sigan actuando todos los recursos de los que nos hemos dotado para promover la integridad impulsar la transparencia y combatir la corrupción siguen plenamente vigentes y activos vigentes y activos con respecto a la enmienda presentada por el grupo euskal herria bildu

recoge cuestiones que están a su vez integradas plenamente y claramente en la directiva de la unión y que por lo tanto deberán ser cumplidas e implementadas y estamos plenamente de acuerdo con ellas no tenemos ninguna duda al respecto donde nos surge la duda

punto lo ha dicho el señor rico ha vuelto a rescatar la proposición de ley que ha sido debatida

estamos de acuerdo claro pero el problema reside en el momento en que

que marca que ustedes recogen en su enmienda cuando hay que plasmarlos en medidas que sean que tengan una

que tengan una carga es decir en medidas legales cuando hay que trasladarlas al boletín

problema que tenemos que tienen los juristas es el problema que podemos

hay que llevarlo al boletín y para eso hay que cambiar y tocar muchas cosas de ahí la complejidad jurídica a la que hacía referencia

y nos mantenemos en esa posición sí que es cierto que tenemos competencias para generarla

no es menos cierto que para darle el contenido que la directiva requiere es donde no tenemos todas las competencias ojalá ojalá pero no es así y no nos queda otra que entendemos como lo más razonable en este punto esperar a esa transposición por parte del gobierno del estado finalizo

estimamos que es un acuerdo razonable y que entra dentro de la lógica del objetivo que todos y todas buscamos que es implementar las medidas

gracias señora presidenta buenos días de nuevo en primer lugar quiero manifestarles que nos alegra sobremanera y que nos congratulamos de que el partido popular ciudadanos

y que por fin estemos viendo iniciativas para tratar un cáncer autodiagnosticado o quizá sea más preciso decir un

en cualquier caso nos parece muy conveniente la iniciativa que hoy han traído a este pleno señor gordillo

por algún caso de corrupción dicha persona goce de todas las protecciones que hoy solicitan y por ejemplo no les ocurra como a ana garrido denunciante de la trama gürtel en el ayuntamiento de boadilla del monte que desde entonces

en segundo lugar quiero decirles que nos llama poderosamente la atención la respuesta que dio el pasado doce de noviembre la señora consejera de autogobierno a raíz de la interpelación del grupo proponente y llama la atención porque justamente el pnv sí que ha sido investigado o está siendo investigado por un sinfín de casos de corrupción alonsotegi balenciaga bidegi caso de miguel montones

hizo en las que manifiesta que el fraude y la corrupción no suponen una verdadera preocupación ciudadana

cree que la sociedad no está cansada de la corruptela de la vieja política y aspira a limpiar las instituciones está quizás intentando desviar la atención de los casos de corrupción de su partido qué interés tiene en que no se proteja a las personas denunciantes quizás hacer saber a las personas que en algún momento tengan motivos para poder denunciar casos de corrupción

un estudio publicaba que el cuarenta por ciento de la población de la comunidad autónoma vasca coincidía en la percepción de corrupción en el gobierno vasco esto ocurrió en dos mil catorce dejo a su imaginación el porcentaje actual por tanto en vista de este extraño

esta iniciativa y todas las que se traigan para eliminar los casos de corrupción las apoyaremos por otro lado la enmienda que presenta pnv pse con pp ciudadanos creemos que se queda descafeinada con lo bien que iba en un principio la iniciativa inicial no obstante la apoyaremos

porque estamos hablando del cumplimiento de una directiva europea genérica que aboga por la protección de las personas que informen sobre infracciones de derecho de la unión

a esto podríamos llamarle echar balones fuera porque que venga una futura ley no quiere decir que no utilicemos los recursos disponibles actualmente

y eso es lo que creemos desde vox muchas gracias eskerrik asko martínez andrea elkarrekin podemos ezker anitza taldearen ordezkaria soto jauna zurea da hitza

egun on gracias señora presidenta consejeros consejeras no voy a

la corrupción y la práctica de la corrupción en el sistema político sin embargo sí creo que hay que incidir en lo importante que resulta crear instrumentos de control por parte de las administraciones públicas para que esto no sea así además de porque es una exigencia propia en términos democráticos también lo es

lo expresa de una mayor manera o con mayor contundencia nos lo pide gracias a personas con la denominación de alertadores que es un término derivado básicamente de la legislación norteamericana

a alertadores hemos sabido en nuestro país de casos de corrupción que algunos de ellos ya se han mencionado en este debate como el caso

más cerca el escándalo de las ope del mismo modo también que incluso

casos como las niñas y los niños robados en clínicas hospitalarias estatal este punto que debatimos aquí en cualquier caso no es nuevo como decía es algo que en otros países haciendo un ejercicio comparado ya se lleva

en esta cámara se ha debatido en más de una ocasión de hecho nuestro propio grupo parlamentario presentó en el dos mil diecinueve a razón también del trámite de la directiva que se ha mencionado aquí una proposición de ley que no fue aceptada y

con un criterio desfavorable por parte del gobierno vasco que no se refería en ese informe tanto a la necesidad de esperar a la transposición de la directiva sino que más bien hacía mención y leo literalmente a que en un instrumento idóneo para proporcionar la incorporación de estas medidas es decir

debiesen de incorporarse en la proposición de ley sobre transparencia y participación ciudadana

a la que hacía mención el criterio desfavorable del gobierno nuestro grupo parlamentario planteó determinadas enmiendas entre ellas por ejemplo una

recoger en un buzón de denuncias aquellas que tuviesen carácter anónimo no fueron aceptadas estas enmiendas tampoco por parte de los grupos parlamentarios que sostienen

el partido popular se abstuvo razón por la cual tampoco

tramitarse porque si no sí hubiese podido tramitarse de ahí que nos resulte un tanto contradictorio

hoy aquí haya planteado incluso la posibilidad de que su propio grupo plantee una proposición de ley adelantándose incluso a la transposición de la

el punto al que han alcanzado con acuerdo con los grupos parlamentarios que sostienen al gobierno teniendo en cuenta además que la proposición de ley que nosotros planteamos en el dos mil diecinueve era básicamente una iniciativa calcada a la directiva

de esperar a la transposición de la directiva hasta que esto suceda no dar pasos en la línea del trámite de una

en el informe desfavorable del gobierno vasco no se utilizó este argumento para desdeñar nuestra iniciativa en su momento sino que las iniciativas que planteamos fuesen

y es que en términos económicos el hecho de la corrupción supone cifras astronómicas con las cuales se podría

pública relevante pero sí voy a hacer mención a algunos datos

ethics que decía que el treinta y seis por ciento de los trabajadores y trabajadoras que hicieron públicas irregularidades sufrieron represalias

en el dos mil diecisiete afirmaba que el ochenta y uno por ciento de los europeos no informan sobre casos de corrupción cuando los conocen y según

de oficinas antifraude aquí no tenemos en cataluña sí la mitad de los casos de corrupción son denunciados ciudadanos solo el diecinueve por grupos políticos creemos que es una evidencia con respecto a las represalias que se dan que es necesario dar protección a todos aquellos alertadores que ponen en conocimiento de las autoridades los casos de corrupción y creemos en este sentido

que llegue a esta cámara sea más descafeinada o

tiene que ser apoyada por parte de nuestro grupo parlamentario en este sentido decir que desde luego apoyaremos la iniciativa la enmienda por parte de eh bildu la planteada por parte de eh bildu

gobierno transaccionada con el partido popular porque creemos que en cualquier caso aunque nosotros ya planteamos en su momento la posibilidad de que desde una proposición de ley se adelantaran los tiempos

en la dirección de poder dar protección a los alertadores bienvenida sea y

me voy a alargar demasiado sí que consideramos

que es de vital importancia el establecimiento además de los instrumentos que figuran en la propia directiva

el instrumento que figura en la enmienda planteada por eh bildu que es la oficina antifraude sí que creemos que existen elementos y competencias para poder llevarse a término en nuestro territorio y creemos que podíamos habernos

instrumentalización y puesta en práctica de herramientas que permitieran combatir lo que es las represalias que se generan

necesario que los poderes públicos y que los parlamentos nos comprometamos con el desarrollo de toda medida que pueda prevenir la corrupción sobre todo eventualmente lógicamente sancionar los casos que se produzcan efectivamente

era más ambiciosa evidentemente pero bueno yo creo que el acuerdo al que hemos llegado y me gustaría agradecer de nuevo a los portavoces de los dos grupos que sostienen al gobierno

un acuerdo yo creo que sensato y razonable y nos gustaría haber ido más lejos evidentemente pero al final es el acuerdo al que hemos podido llegar también con el gobierno

es de acuerdo vamos a hacerlo así vamos a ir por pasos vamos a hacerlo por pasos como dicen ustedes pero vamos a hacerlo vamos a hacerlo y yo creo que esta sería una cuestión en la que los grupos de la cámara podrían convenir o podría haber un amplísimo consenso en esta cámara para sacar adelante una ley o

qué contenido van a tener esas disposiciones pues mire el contenido que va a tener eso

en empresas y en administraciones sobre todo obligatoriamente en empresas con más de cincuenta trabajadores y en municipios con más de diez mil habitantes como mínimo esos tendrán la obligación de tener cauces de denuncia efectivas y que la identidad de las personas denunciantes jerarquía de cauces de denuncia unas nuevas normas que incluyan nuevas categorías de personas personas al servicio de las administraciones funcionarios voluntarios trabajadores en prácticas

un ámbito de aplicación mucho más amplio que no se quede solamente en la contratación pública

medidas de apoyo y protección a los denunciantes muy importante y algún grupo lo ha recordado personas que en su momento hicieron denuncias y que lo cierto es que

o que son muy desincentivadoras para otras personas y finalmente obligación de información para los poderes públicos y las empresas

de tres meses que establece la directiva como digo efectivamente vamos a hacerlo como

nacional ya se ha anunciado ya lo ha hecho la ministra se ha recordado en esta cámara

pero sobre todo vamos a hacerlo decía el señor rico hombre es una cuestión muy compleja efectivamente y solamente hay un estado que ya da por

efectivamente la directiva sí cuando se estableció la directiva había ya seis estados en la unión

como ha dicho el señor rico muy bien se nota que es jurista

que tiene distintas digamos aristas que lógicamente hay que acotar pero yo sí quería terminar esta intervención con una cuestión y es que recuerden señorías que son juristas los dos portavoces también consignadores

de la transaccional que como toda directiva aquí se aplica también finalmente el derecho de la unión europea y recuerdan ustedes que toda directiva

incondicional clara y suficientemente precisa pues puede ser con éxito alegada ante los tribunales sin necesidad de norma de transposición nacional por eso es bueno que aquí se actúe coordinadamente parlamento nacional gobierno nacional gobiernos autonómicos y que se establezca una transposición adecuada por qué porque si no acabarán siendo los tribunales los que a lo mejor eventualmente interpretando ciertos artículos de la directiva acaben dando salida

a la consejera que tiene un extraordinario equipo jurídico que ponga gente ya desde ahora yo creo a revisar la directiva por si acaso efectivamente

y no contamos con una transposición adecuada qué consecuencias habría sobre todo para la propia administración autonómica pero bueno

vamos a hacerlo así pero señorías vamos a hacerlo muchas gracias eskerrik asko gordillo jauna

del micrófono yo quiero agradecer la disposición y el tono que

cuestiones tenemos que lanzar un mensaje muy claro y evidente a la ciudadanía y es que se sigue trabajando continuamente por acabar con casos que por supuesto hacen un daño a todos los ciudadanos y ciudadanas del lugar donde suceden esos casos de corrupción

un daño terrible a quienes queremos estar en política para dar lo mejor de nosotros mismos que

y por supuesto que jamás hemos pensado en llevarnos nada que no sea nuestro y yo creo que cuando en ocasiones estos debates son utilizados para

hacemos un ejercicio que en lo único que redunda es en nuestra contra yo me felicito de que hoy este parlamento una vez más haya sido capaz de tener un debate como el que hemos tenido

otra pequeña digresión en con respecto a la posición sobre el turismo de euskal herria bildu porque

periodista conocido alguna crítica a ese respecto a reprochar a euskal herria bildu una postura contraria al turismo eso supone

de decir lo que no has dicho y rebato lo que no has dicho lo cual es mucho más sencillo que rebatir lo que directamente has dicho

garrantzitsua gizarte osoari es verdad y antes hacía referencia a que

registrados en el valga la redundancia registro pertinente del gobierno vasco y es difícil saber ese gap en cuánto se cuantifica por eso precisamente hoy venimos a pedir un informe

competente en el ámbito de la inspección en este ámbito

y dimensionar un problema todos y todas sabemos que existe una oferta la ley determina o la llama clandestina es decir aquella que no está regulada no está inscrita en el registro y aquella que presuntamente o muy posiblemente

obligaciones fiscales que acarrea esta actividad nosotros partimos de una aproximación y el hecho de que hayamos

rumores o sensaciones sí que podemos tener algún indicio pero es un indicio que cabe formularlo como

que deberá ser confirmada precisamente por un estudio de campo

también a iniciativa de este parlamento pero voy a dar algunos datos en estos momentos en el registro del gobierno vasco hay registradas voy a redondear las cifras tres mil trescientos pisos turísticos y algo más de seiscientos habitaciones de uso turístico lo que supone

pisos y viviendas de uso turístico en total en la plataforma de airbnb a través de un servicio que funciona online

que permite totalizar los datos de la oferta de esta plataforma en un determinado territorio nos encontramos

la realidad es que no todas las habitaciones y pisos de uso turístico se ofertan exclusivamente a través de esta plataforma a pesar de ser la mayor y la más conocida

refiriendo en mi intervención se detectó que más o menos a las

un veinticinco por ciento más de viviendas que se anunciaban en otras plataformas sin estar anunciadas

anunciadas en varias directamente aplicando esa tasa del veinticinco por ciento que ha podido variar

son una estimación pero aplicando esa lógica hoy nos encontraríamos

de seis mil doscientos viviendas y habitaciones hablo en todo momento por tanto

nos lleva a que esa diferencia a la que hacía mención pudiera alcanzar el número de dos mil doscientos por tanto cuatro mil legales dos mil doscientos clandestinas

una de cada tres o un treinta y cinco por ciento ilegales los datos pueden ser menores luego habrá que pormenorizar es verdad que también hay algunas viviendas anunciadas que no son de particulares o no encajarían exactamente en el concepto de vivienda de uso turístico estos datos evidentemente

que los datos son suficientemente preocupantes como para exigirnos a todos y todas que hagamos lo que hoy precisamente vamos a hacer que es encargar a quien corresponda un estudio analítico que nos permita

que es un poco tautológico porque realmente pide al gobierno que haga lo que efectivamente

que tiene voluntad de hacer que es en la medida que se hayan detectado y afloren a través de este

podrá acudir a esas viviendas para tratar de sacarlas del mercado

a actuar de una forma sancionadora que también la ley le permite

un beneficio colateral redirigir y hacer lo que esté en su mano para redirigir esas viviendas

en el mercado de alquiler turístico al alquiler residencial que está bien necesitado de ello gaurko

entre los incrementos y la acción de los pisos turísticos y el problema del acceso a la vivienda

nuestra coalición que el incremento de las viviendas turísticas supone un aumento de los precios de los alquileres y por lo tanto es un problema para garantizar el derecho a la vivienda un derecho subjetivo según la ley de vivienda pero que como todas sabemos pues no existen no es real en la práctica ese derecho para muchas personas

el problema es cierto es mayor en determinadas ciudades yo creo que donostia

para euskadi según un estudio realizado por investigadores de la upv un estudio riguroso y publicado en la prestigiosa revista científica el incremento de las viviendas

de los alquileres un estudio cuyo objetivo principal era precisamente analizar el impacto del aumento de la oferta de pisos turísticos en los alquileres en donostia se trata de la ciudad vasca donde el problema es mayor y es verdad que este fenómeno que no será de manera generalizada lógicamente en todas las ciudades

pensamos que es un problema serio con consecuencias de primer orden para el acceso a la vivienda en donostia los pisos turísticos ya se han convertido en un auténtico problema que resta mucha oferta residencial esta es una frase que no

la hacemos nuestra no es una frase que yo haya tomado de alguna asociación de vecinos aunque nos consta que numerosas asociaciones de vecinos la hacen suya no es una frase que hayamos tomado de una plataforma aunque también se la hemos escuchado a algunas plataformas ciudadanas

mario yoldi director de planificación de vivienda del gobierno vasco hace algunos años ya

desde nuestro grupo consideramos que sí que es un problema importante y por ello nuestra coalición viene haciendo numerosas propuestas sobre todo en el ayuntamiento

algunos años la principal hipótesis de este estudio al que he hecho referencia era que el aumento de la oferta destinada al turismo en donostia

yo creo que esto ya es reconocido por todo el mundo y a la vista de los resultados obtenidos concluían que la hipótesis que ellos marcaban era cierta los resultados muestran decían en ese estudio con datos y de manera empírica que un aumento de una unidad en la desviación típica

del siete coma tres por ciento del precio de los alquileres a largo plazo

sobre donostia insisto las conclusiones es verdad son coherentes con otros estudios realizados en diversas ciudades europeas también estadounidenses

y diversas ciudades por ejemplo de la costa andaluza los efectos nocivos

por un lado la mayor rentabilidad esperada hace que parte de la oferta de alquiler

de precios por otro lado la posibilidad de maximizar ingresos derivados del mayor aprovechamiento de la vivienda hace aumentar también su valor como inversión encareciendo con ello los precios nuevamente y dificultando por tanto

a quienes la necesitan no como una inversión sino como una necesidad que es lo que se debería tratar de resolver esto está pasando en euskadi de manera especialmente grosera como decía en donostia desde hace años

así como la mayor presencia de visitantes año a año está provocando cambios importantes nosotros no vamos a decir que todos esos cambios son negativos nunca hemos mantenido esa posición pero hay

se están destinando al alquiler turístico lo que está provocando el encarecimiento de los precios tanto para alquiler como para compra y por tanto también la menor oferta de pisos para vivienda

referencia el señor casanova controlan buena parte de ese mercado

es supuestamente un modelo económico basado en la producción y consumo compartidos y en la colaboración ciudadana pero en la práctica real sabemos

no siguen estos principios por dar algunas cifras

en donostia casi el veinticinco por ciento una cuarta parte eran de los diez principales anunciantes y en el año dos mil diecinueve los tres principales anunciantes ofrecieron entre ellos tres más del doce por ciento de los pisos turísticos por eso nosotros estamos de acuerdo con la elaboración de ese estudio integral sobre la oferta real de pisos y habitaciones de pisos turísticos que debería servir para actualizar el mapa del cumplimiento de los requisitos que la ley y la normativa marcan pero pensamos que no solo para eso

y es real pensamos que hay que impulsar también otra serie de cuestiones que incluíamos en nuestra enmienda desde el sector público

entre el desarrollo del sector turístico y sus implicaciones positivas que como decía antes las tiene económicas sociales culturales

que necesita que la vivienda sea un derecho y no un bien inaccesible por su coste inasumible para muchas familias y personas que es lo que actualmente está pasando junto a las políticas en materia de vivienda por lo tanto se deben impulsar en nuestra opinión y desarrollar medidas específicas relacionadas

en los precios de las viviendas y para evitar por lo tanto que suponga un elemento contrario al acceso a la vivienda como derecho y como necesidad

etcétera algunas de estas cuestiones las incluíamos en nuestra enmienda de hoy otras no

y queremos insistir en la necesidad y defensa de las mismas como vienen haciendo nuestras compañeras en el ayuntamiento de donostia donde como he dicho anteriormente nos parece que el problema es especialmente preocupante proponemos también

de donostia a disponer de los medios necesarios para la búsqueda y control de las viviendas y habitaciones turísticas ilegales y para que puedan contar con un plan también de asesoramiento que permita incorporar esas viviendas al parque de alquiler residencial

se puso en marcha una unidad dentro de la policía municipal para esa vigilancia y control lamentablemente parece que ya no existe esa unidad en estos momentos es importante que los propios municipios afectados puedan contar

turísticos porque están más pegados al terreno tanto en el lado de la recopilación y análisis de datos como en el de la

in situ está claro que con un inspector o con veinte los resultados que se obtienen no son los mismos y está claro

es fundamental nosotros pensamos que no se está haciendo con la intensidad que sería necesaria me gustaría poner un ejemplo entre los años dos mil quince y dos mil diecisiete airbnb que

ha aumentó considerablemente su oferta con unos ochocientos pisos turísticos más anunciados

paralelamente se cerraron por actuación inspectora ciento veintiocho pisos

en el mismo periodo esto significa que en ese periodo cada vez que un piso turístico ilegal desaparecía aparecían cinco más en la ciudad por lo tanto concluimos

es insuficiente nosotros quisiéramos pedir la votación por puntos de la transacción a la que

ese estudio no se recogen las cuestiones que nosotros planteábamos pero desde luego no nos vamos a oponer a la iniciativa pero sí queríamos pedir esa votación por puntos para abstenernos en el segundo

algo insuficiente ante este planteamiento que hago de que no se

no tenemos especiales problemas con el pero sí pensamos que no debiéramos hacernos trampas al solitario los propietarios de pisos turísticos mayormente optan por ese modelo porque les da

un efecto más limitado en cualquier caso si se acepta esa

gracias presidenta pues mire yo por centrar el debate esta

si creen que se va a eliminar la problemática que existe en el país vasco sobre

pues no va a ser solo con los pisos turísticos es un problema más profundo lo que sí puedo decir es que he visto la transacción a la que han llegado voy a votar a favor porque creo que es importante que tengamos los datos y la fotografía real de lo que está sucediendo con los pisos turísticos y sobre el turismo quiero decir que es un sector que nosotros apoyamos todos queremos un turismo ordenado

y que haga prosperar la economía de nuestra tierra pero esto no es una caza de brujas es importante que quien tiene un piso turístico lo declare y pague los impuestos pertinentes a tener ese piso turístico pero no se trata

de los contratos de vivienda de alquiler están ligados al ipc y por lo menos la revisión de los contratos que vaya a haber

va a ser al alza y seguramente aumenten una media de cincuenta euros pero no me quiero meter en el debate

influye mucho la inflación en el valor del precio del alquiler

ese debate lo que corresponde hoy es hablar de los pisos turísticos y de la necesidad de rehacer aquel informe que se hizo en el año dos mil diecisiete para saber cuál es la fotografía real

de lo que tenemos entre manos en el país vasco y claro que san sebastián es una ciudad que está sufriendo el turismo masivo pero se trata

que nos reporte más económicamente a los vascos sin llegar a ejercer una caza de brujas hacia quienes vienen aquí simplemente que quieren disfrutar de esta tierra que es una maravillosa tierra y que también tienen derecho a venir aunque no tengan unos recursos económicos

sí gracias presidenta y buenos días

planteado conjuntamente con el grupo nacionalistas vascos ante la iniciativa que habían presentado los socialistas consideramos que el turismo es un sector clave para la economía vasca porque supone el seis coma nueve por ciento del producto interior bruto supera en dos mil diecinueve por primera vez

trabajan en este sector en dos mil diecinueve el año previo a la pandemia nos visitaron casi cuatro millónes de personas lo que suponía un incremento respecto a dos mil dieciocho del tres coma dos por ciento estamos hablando de más de ciento veinte mil nuevos visitantes incrementándose también las pernoctaciones en un tres coma ocho por ciento

tanto de las entradas como de las pernoctaciones en los establecimientos hoteleros en el conjunto de ese año dos mil veinte y se registra un descenso del sesenta y uno coma uno por ciento

en las pernoctaciones respecto a dos mil diecinueve el mes de diciembre de dos mil veinte concluía por ejemplo con un cuarenta y uno coma uno por ciento de los establecimientos hoteleros cerrados todos los días del mes y antes del verano este mismo año dos mil veintiuno ya tuvimos ocasión

y sus perspectivas para este año dos mil veintiuno la pandemia por tanto ha afectado de forma muy contundente al turismo vasco

todos sus subsectores han padecido su impacto y muchos de ellos sin prácticamente ingresos durante todo el año dos mil veinte y gran parte

por eso el departamento de turismo comercio y consumo volcó el esfuerzo en la gestión de los programas de ayudas al sector por importe de ochenta y tres coma uno millónes de euros

al sector turístico mil seiscientos ochenta y nueve solicitudes en el programa de ayudas para el sostenimiento del sector turístico vasco

de los programas ordinarios de comercialización de productos turísticos de proyectos territoriales turísticos y de ayudas al emprendimiento y a la mejora de la competitividad de las empresas turísticas el consejero javier hurtado en su comparecencia de hace unas semanas

y cómo a los fondos ordinarios se sumaban casi veinticuatro millónes de euros de fondos europeos para las inversiones en planes de sostenibilidad turística en destino

y otros tres coma tres millónes de euros para la rehabilitación del patrimonio histórico turístico de uso público también nos explicó el consejero el esfuerzo de inversión destinado a afrontar diferentes intervenciones en las zonas de actuación preferente

en la mejora de la competitividad y en la transformación del sector turístico vasco y así la estrategia de sostenibilidad turística en destinos inyectará sesenta y siete

durante tres años hemos estado y estamos en un modelo de turismo sostenible de turismo responsable de estrategia y gestión turística que además

de naciones unidas y en el sector del turismo un sector clave para la economía vasca se encuentran entre otros aspectos las figuras alojativas de las viviendas y habitaciones de uso turístico figuras cuya regulación aparece en dos mil dieciséis

por la utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación aunque también debemos recordar que en dos mil ocho la ley de turismo suprimió este tipo de alojamientos porque no

debemos considerar también el hecho de que las viviendas y las habitaciones para uso turístico son

y para iniciar su ejercicio es necesario presentar una declaración responsable que conlleva su inscripción en el registro de empresas y actividades turísticas de euskadi así como ajustarse

en el desarrollo de la ley en el decreto concretamente ciento uno de julio de dos mil dieciocho y en el debate parlamentario de dos mil diecisiete sobre la elaboración también de un estudio integral sobre las viviendas y habitaciones de uso turístico no disponíamos entonces en aquel debate de ese decreto ciento uno de tres de julio de dos mil dieciocho aprobado por el gobierno vasco y este es un hecho importante

que regula esta actividad atendiendo a diferentes realidades

diferentes principios la aparición de nuevos canales electrónicos de comercialización que permiten poner en relación a las personas titulares de los bienes o servicios turísticos

la necesidad de cumplimiento de la normativa aplicable tanto la urbanística como la fiscal

y el principio de autonomía municipal y el procedimiento establecido para esta actividad es el de la presentación de la declaración responsable de inicio de actividad cuya inscripción se valida por el personal técnico de las oficinas territoriales de turismo se inicia por la administración turística el procedimiento de comprobación

y es entonces cuando el decreto establece que se debe solicitar el informe municipal que será preceptivo y vinculante otorgando un plazo de tres meses a los ayuntamientos para remitirlo

son periódicas pero es verdad que los procedimientos de comprobación tanto por parte de la administración turística como de la administración municipal suelen ser largos en el tiempo porque hay que dar cumplimiento a las garantías jurídicas de las personas físicas o jurídicas que realizan este tipo de actividades y los procedimientos de comprobación e inspección se inician por dos vías bien de oficio

anónimas o formales a través de los canales establecidos adicionalmente también hay asociaciones del sector que ponen en conocimiento posibles irregularidades que se comprueba en inspección

casanova actualmente se encuentran registradas en el registro de empresas y actividades turísticas de euskadi un total de trece mil trescientos ochenta y uno viviendas particulares para uso turístico

también es verdad que las altas y bajas en el registro de viviendas de uso turístico ha sido intenso y continuo prácticamente al treinta por ciento de las que alguna vez estuvieron registradas ahora ya no lo están bien bien nos parece interesante importante el acuerdo al que hemos llegado sobre la elaboración en seis meses de ese estudio integral

del sector y comprobar que se están cumpliendo los requisitos tanto de la ley como del decreto que lo regula y además entendemos necesario que se continúe como no podía ser de otra manera

de la oferta clandestina y que además se implementen herramientas como ese buzón de denuncias de la ciudadanía que faciliten la información y además facilitar perdón la información

para que puedan conocer esas alternativas y ventajas del sector del alquiler residencial el departamento

siempre ha considerado positivo analizar y evaluar constantemente los diferentes sectores que componen la cadena de valor turístico en euskadi y también

debiendo por supuesto inspeccionar y sancionar a quienes no cumplan con lo establecido en la normativa pero los socialistas vascos partimos

pero partimos de premisas diferentes a las planteadas por euskal herria bildu para llegar al objetivo de elaborar ese estudio

de usos turísticos porque euskal herria bildu concluye que solo con ver las plataformas de comercialización

además la correlación que hace bildu de este tipo de alojamientos con la masificación turística o

no lo compartimos y me explico primero porque entendemos que de la lectura de las ofertas de las plataformas de comercialización no se puede concluir que son cientos

de uso turístico que no cumplen los requisitos de inscripción en el registro porque los propietarios buscan en las plataformas posicionar su producto de la mejor manera

o anuncian la misma vivienda o habitaciones en las diversas plataformas y de forma diferente

para mejorar su atractivo estamos hablando de duplicar o triplicar esas ofertas

en segundo lugar porque en euskadi no existe un problema de masificación turística puede haber picos puntuales o esporádicos en zonas o con recursos concretos

porque no cualquier vivienda o cualquier habitación puede ser alojamiento turístico ni por normativa autonómica ni por normativa municipal y en tercer lugar con respecto

como factor determinante en el incremento del precio del alquiler de las viviendas de uso turístico las habitaciones de uso turístico decirles que

no tienen en cuenta múltiples factores que afectan a ese precio del alquiler de la vivienda y eso también es importante hay quien ha hablado de un estudio de profesores de la upv

las plataformas a ese incremento de alquiler de las viviendas y no tienen nada que ver con el estudio que han realizado los profesores yo no quiero hacer el encontronazo entre diferentes

no analizar que hay otros factores como el tema de la demanda del alquiler o el descenso del desempleo o las dificultades por la compra o por el que lleva al incremento del alquiler la escasez de viviendas en alquiler y por último el incremento del alquiler vacacional me parece que es ir al trazo grueso

a la realidad de lo que estamos pretendiendo hacer gracias eskerrik asko corcuera andrea euzko abertzaleak grajales jauna zurea da hitza

azkenean enplegua eta eskaintzaren kalitatea hondatuko direlako pero ha llegado el momento señor consejero como le dije en su última comparecencia de dejar de lado lo urgente la pandemia en este caso para seguir trabajando en lo que es importante es decir hay que volver a centrarse en toda la problemática

antes de marzo de dos mil veinte y a todos los retos en los que se venía y se ha seguido trabajando durante esta triste etapa en la que no lo olvidemos la pandemia ha afectado de forma muy contundente al turismo vasco con todas sus subsectores afectados y muchos de ellos

y gran parte de dos mil veintiuno no olvidemos la importancia que tiene el turismo no solo desde el punto de vista del producto interior bruto sino de su capacidad para generar empleos

asimismo desde la colaboración entre instituciones hay que seguir potenciando marca de país utilizando nuestras fortalezas y reforzando nuestras debilidades para que euskadi sea conocida

y calidad a nivel mundial estamos hablando de economía de competitividad de puestos de trabajo pero también de vertebración del territorio de sostenibilidad social económica y medioambiental en definitiva de una manera de entender la vida de estar en el mundo por lo tanto la transacción a la que hemos llegado es reflejo de esta necesidad y de este punto de vista debemos conocer cuál es la fotografía actual del sector y comprobar que se cumple con las normas para saber cómo se va conformando

cada vez más estable asimismo todas las administraciones implicadas gobierno ayuntamientos deben seguir controlando para evitar que prolifere la oferta clandestina y si fuese necesario como décimos en esa transacción reforzarlo para lo cual por desgracia

tiene cintura para enfrentar este tipo de retos con capacidad

y finalmente el gobierno deberá informar de las posibles ventajas que el alquiler residencial pudiera tener

turismo de masas es un fenómeno relativamente nuevo que requiere de una atención especial y continua más en estos tiempos de revolución tecnológica que nos ha traído fenómenos inimaginables hace apenas unos años pero este país hace años que atrae a gentes desde otras tierras hace más de doscientos años el berlinés wilhelm

hoy día a la universidad de su ciudad de berlín escribió

un pueblo que ha conservado por una larga serie de siglos su primitiva lengua y en gran parte también su antiguo régimen y costumbres según la feliz expresión de un moderno escritor se ha sustraído tanto a la mirada del observador como a la espada

ni estamos sustraídos a la mirada de observador ni estamos dispuestos a aceptar espadas de ningún tipo

ni en madrid esto es el país vasco lejos de ser una potencia turística de primer orden pero una región a la que le van bien las cosas que poco a poco se ha ido situando en el mapa

según el instituto vasco de estadística en dos mil diecinueve recibimos casi dos millónes de turistas extranjeros que se gastaron algo más

hablamos de turistas que contratan servicios con agencias de viaje llegan a nuestros aeropuertos alquilan coches o viajan en taxi y transportes públicos comen en nuestros bares y restaurantes

locales y por supuesto pernoctan en nuestras ciudades lo que para bildu es masificación y sobreexplotación turística para vox es el tres por ciento

en alojamientos en hostelería y como guías turísticos

y no olvidemos la que está cayendo en el sector en gran medida como consecuencia de las fuertes restricciones impuestas en y fuera de esta región un motivo para evitar legislaciones imposibles de cumplir e infranqueables trabas burocráticas para quien tenga la posibilidad

legal y razonable a sus propiedades antes de realizar estudios antes de fomentar campañas sobre las bondades del alquiler residencial antes de perseguir al infractor sería justo demandarles algo de autocrítica y podríamos empezar por armonizar las diferentes normativas en vigor y a los ejemplos me voy a remitir

así por ejemplo en bilbao solo puede haber una vivienda de alquiler para uso turístico por edificio y esta tiene que estar en la primera planta mientras que por ejemplo en san sebastián se ha dividido la ciudad en zonas estando en algunas completamente prohibido ofertar viviendas o habitaciones turísticas lo cierto es que hacerlo es una yincana burocrática que frena más que anima

en vox creemos que no es el momento de perseguir a quienes pretenden vivir del turismo a quienes propician que otros reciban ingresos de los turistas que nos visitan y resulta absolutamente inoportuno demonizar a quienes eligen como opción de negocio las viviendas y habitaciones turísticas aquí se habla en todo momento de perseguir de vigilar el cumplimiento de las normas en ningún momento se hace autocrítica ni se le está dando valor al sector

pero por otro lado los partidos de gobierno nos sacan a la luz el buzón

esa donde cabe de todo desde la verdad hasta las más torticeras y sucias intenciones creemos que este no es el camino para poder solucionar este tipo de problemática eviten insoportables burocracias den posibilidades reales y las viviendas turísticas clandestinas será fácil que desaparezcan serán una anomalía

no generen un problema inexistente y dejen de señalar con el dedo a quienes

y animen a las familias y a autónomos a emprender para que el país vasco siga creciendo como potencia turística gracias eskerrik asko martínez andrea

eguerdi on berriro pues ojalá el problema de la carestía de la vivienda y de los precios del alquiler fuera exclusivamente

entonces quitamos los pisos turísticos y arreglamos uno de los primeros problemas que tiene la sociedad actual

global es que eso no lo hemos dicho nosotros nosotros lo que hemos dicho es que está relacionado no es lo mismo estar relacionado que ser la única causa y efectivamente está relacionado el señor hernández

por ciento en la subida de los precios del alquiler porque está relacionado

como donosti donde hasta el dos por ciento del parque de viviendas está destinado a piso turístico

ayudar no ayuda agravar agrava y habrá que determinar en qué medida pero los únicos estudios de los que disponemos si hay otros que se pongan encima de la mesa dicen que sí que efectivamente agrava y otra cuestión señora

yo no sé exactamente cuántos pisos están fuera de la legalidad o en la

y con transparencia he dicho en base a cuando se hizo el anterior informe en el año dos mil diecisiete

seiscientos cincuenta y siete pisos una vez hecho la expurgación digamos de los duplicados de los que de varia manera y tal cuando en airbnb había dos mil ochocientos

yo he hecho una regla de tres y la he formulado como una hipótesis con mucha prudencia porque efectivamente puede haber nuevos factores

dentro del conjunto de plataformas desde la prudencia lo que le estoy diciendo es que la vez pasada había un veinticinco por ciento más de oferta de la que se reflejaba

nos encontraríamos ante casi un tercio de las viviendas no es que no puedan cumplir sino que no los cumplen

no cuadran los números de las registradas con las ofertadas eso es a lo que me refería

para este acuerdo al resto de grupos que van a votar favorablemente también su actitud y yo creo que la parte nuclear del acuerdo de hoy prácticamente tiene un respaldo unánime no solo de esta cámara sino del conjunto de agentes interesados me atrevería a decir

asociaciones que comercializan pisos turísticos dentro de la legalidad porque no creo que a nadie le moleste más

actuando dentro de la legalidad pagando unos impuestos y pasando unos trámites que otros se pasan sí pero por

reclamando un mayor rigor en el control de esta oferta y que poco menos que han dicho que hay barra libre cosa que no sé hasta qué punto puede llegar a ser así pero en todo caso

que dedique a unos profesionales al análisis que es un análisis que es costoso que casi es una

todas las páginas web y demás pero bueno una vez tengamos esos resultados es cuando ya

en un debate político distinto en el que cada cual interpretará esos datos de una forma u otra pero yo no quería y esto un poco en tanto si en respuesta sino en diálogo con el señor hernández

o en contra esto va de decir que hay un sector económico que tiene una legislación que hay que respetarla que

y da seguridad a quien ofrece el servicio y se trata de sacar

entonces estos informes que se van a realizar nos van a dar certezas y realidades a quienes tenemos que ejercer o que legislar a ese respecto

de la mejora de la economía de un turismo ordenado

sí gracias presidenta yo tan solo para hacer algún comentario porque antes

en primer lugar yo lo que he dicho es que los socialistas vascos no compartimos las premisas

euskal herria bildu en su iniciativa hemos compartido el objetivo de que se elabore ese estudio integral sobre las viviendas de uso turístico y las habitaciones de uso turístico pero mire señor

por otra parte la oferta de viviendas de uso turístico está suponiendo que cada vez sean más las viviendas que desaparecen del mercado de alquileres residenciales lo cual influye de manera directa

hernández lo ha completado con su intervención nosotros queremos decir que

y de las miles de viviendas clandestinas que se saca usted con un estudio

le hace la purga y dice que hay tantos miles o cientos o miles de viviendas clandestinas bueno

en la que los propietarios de estas viviendas lógicamente lo que buscan es posicionar su producto en las mejores condiciones

con formas diferentes para mejorar su atractivo y de igual manera tampoco es inusual que la misma vivienda se oferte en varias plataformas diferentes

no puede concluirse como plantea euskal herria bildu que son cientos o miles las viviendas y habitaciones de uso turístico que no cumplen los requisitos básicos para inscribirse en el registro

cuál es la oferta real en cuanto a la masificación yo quiero decir que en euskadi no existe un problema general de masificación turística no existe

turística podrá haber algunos picos en algunas zonas con algunos recursos concretos en nuestros territorios pero tampoco tienen ustedes en cuenta

que cualquier vivienda en fin se puede convertir en alojamiento turístico porque no es verdad que la capacidad de los pueblos y ciudades para acoger turismo

infinitum dicen ustedes lo cual de forma cada vez más generalizada genera realidades de sobreexplotación turística eso dicen ustedes desde bildu

cualquier vivienda no puede convertirse en una vivienda de uso turístico una habitación de uso turístico

en el registro de actividades de acuerdo a la ley de turismo de euskadi y de acuerdo al decreto ciento uno y ya en cuanto a la carestía de la vivienda miren podemos hablar de estudios de todo tipo el señor hernández ha sacado el de los cuatro investigadores de la universidad del país vasco que además hacen una investigación

del acceso a las viviendas de uso turístico con el incremento de los precios de los alquileres

del impacto de las plataformas en el mercado inmobiliario que se hace en boston con la técnica de variables instrumentales para aislar la parte de los costes de la vivienda que se debe a la llegada de plataformas y que dice que el incremento

provoca el incremento del cero coma dieciocho por ciento en las tarifas del alquiler y el cero coma veintiséis por ciento en el precio de la vivienda lo que digo es que claro andar aquí chocando o contrastando estudios de unos y estudios de otros bueno

declarar como factor determinante en el incremento del precio del alquiler de las viviendas la cuestión de las viviendas de uso turístico las habitaciones de uso turístico porque hay otros factores que considerar y que tener en cuenta y creo que ustedes son lo suficientemente inteligentes como para entenderme perfectamente

hacemos un estudio expreso específico sobre esta cuestión lógicamente se incrementara el alquiler oiga y cuánto en qué

con respecto al factor del incremento en la demanda del alquiler con respecto

mayor capacidad económica para compra de vivienda en qué factor o en qué

y entonces se deriva al incremento de la vivienda en alquiler en qué nivel ponemos las viviendas de uso turístico con respecto a la escasez de vivienda en alquiler en esta euskadi general claro es que hay muchos factores

porque el debate no sé quién lo decía el debate es más genérico y más general si pretendemos hablar del incremento del precio del alquiler de la vivienda o de la vivienda en sí

durante muchos muchos años en los cuales el precio de la vivienda

era desorbitado saben ustedes que entonces no se tenían en cuenta qué era eso de las viviendas de uso turístico ni las habitaciones de uso turístico claro es que hay que concentrar o centrar el debate en lo que realmente importa y es ese estudio integral
de las viviendas de uso turístico y me alegro y eskerrik asko me alegro